cuando recogía un conocido premio él mencionaba tres palabras que hoy hago mías inclusión diversidad y visibilidad

en la inclusión de estas personas y en la construcción de una sociedad inclusiva y en igualdad de oportunidades hemos conocido que se han dado pasos por las administraciones públicas vascas y en concreto el proyecto de ley de empleo público vasco que recientemente ha aprobado el gobierno

con diversidad funcional y en concreto intelectual sabemos que no existen personas incapaces sino entornos inadecuados y por eso todos y todas tenemos mucho camino por recorrer horregatik

pero estas previsiones genéricas tanto de la ley como de la planificación del empleo

que asegure el cumplimiento real y efectivo de esas previsiones de manera que estos colectivos puedan efectivamente gozar del derecho a acceder a un puesto público en el sector público en la administración pública o sencillamente a ejercer el derecho al trabajo y a su inserción laboral en el marco lógicamente de un derecho

en el departamento que tengo el honor de dirigir hace ya meses que venimos trabajando en este programa operativo

de las entidades sectores y asociaciones que trabajan en el ámbito

lo que hemos podido aprender de estos colectivos sobre todo fundamentalmente es que más allá de las previsiones legales un programa operativo que facilite el acceso de las personas con diversidad funcional intelectual en el ámbito de la administración pública no puede centrarse exclusivamente en las ope tiene que

planteamiento integral mucho más holístico mucho más omnicomprensivo

de un análisis previo del papel que estas personas pueden desempeñar en nuestras organizaciones públicas en general y en nuestras organizaciones administrativas en particular y que por supuesto culmine después con una programación bien pautada bien estructurada sobre la tutorización el apoyo que puedan

de manera que su inserción sea lo más armónica posible

ni en estas personas por eso la programación que estamos llevando a cabo necesariamente opera antes durante y después de lo que son propiamente los procesos selectivos antes estudiando muy pormenorizadamente cuáles son las plantillas cuáles son las rpt y qué

que puedan acomodarse o puedan responder a sus características especiales

al perfil de estas personas durante adaptando los procesos selectivos para que estas personas puedan presentarse a los mismos y puedan superarlos

o bien estableciendo turnos aparte o bien estableciendo adaptaciones de pruebas concretas y en tercer lugar estableciendo como antes decía los mecanismos de ingreso en la administración una vez que han superado el proceso selectivo a través de mecanismos de tutorización

se evalúan entre otras cosas en su nivel de desarrollo por el modo en el que tratan y facilitan el ejercicio de derechos por parte de estos colectivos de las personas con discapacidad intelectual particularmente y aquí tenemos un colectivo tenemos un quehacer importante

y una singular responsabilidad de las administraciones públicas y en ello estamos empeñados y en ello utilizaremos todos los recursos humanos y económicos que haga falta efectivamente para hacer efectivo este plan y garantizar el derecho efectivo de estas personas

años demuestra la gravísima situación que vive el estado español que no es otra cosa que una crisis democrática a mi juicio la crisis de quien no cree en la democracia

que destituir el gobierno legítimo disolver el parlament fue un bálsamo para cataluña

gauzak honela ez dakit zer etorkizun ikusten diozun herri qué le va a quedar a este parlamento

aprobar en el senado efectivamente una moción fundamentada en la idea de que aumentar las competencias a una comunidad rompe el principio de igualdad es

aprobar una moción instando a incumplir una ley es inducir a la prevaricación plantear esta moción sin ningún efecto práctico se denomina provocación en realidad

las competencias han supuesto una mejora de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía el cumplimiento

beneficia a todas las personas y no perjudica a nadie ni aquí ni en el estado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eutsi behar zaiola porque en general parece que ha decidido usted cruzar los dedos

de que siguen siendo ustedes influyentes en madrid pero ya va siendo hora de que

repite y lo que incluso altos cargos de su administración dicen una y otra vez que madrid

erantzuteko criminalizan la disidencia criminalizan derechos humanos básicos y además el jefe del estado se permite decir que la ley está por encima de la democracia se permite decir que la ley está por encima de la democracia

ninguna de las alternativas garantiza el respeto que merece el pueblo vasco porque el nacionalismo español ese sí

es hora de articular un bloque soberanista fuerte que garantice mayorías en favor del derecho a decidir y en favor

de la queja que tienen ustedes sobre las inversiones que pueden no llegar a euskadi en estos últimos días pero

hablar yo creo que su partido se ha sentido más cómodo muchas veces negociando

yo creo que hay ejemplos claros que se quedan ahí en el tintero como pueden ser las líneas de cercanías

de comunicación que tiene enkarterri por falta de inversión en la línea bilbao santander para comprobar que hay una articulación del territorio y de la movilidad sostenible que nunca han estado las prioridades que han tenido ustedes para negociar con el gobierno pero creo que hay una agenda que hay que presentar frente a esta agenda una nueva agenda que hay que llevar

a las legislaturas del estado y que es la agenda social vasca que elkarrekin podemos quiere plantear

la política al servicio de las personas en euskadi con medidas que mejoren la vida de la gente como han sido el salario mínimo interprofesional o de las pensiones y que eso es

cuando hay que influir en la agenda política en euskadi y en madrid y a mí me resulta sorprendente que a pesar de que

el hecho de que no hayan salido adelante los presupuestos más sociales y progresistas de la última década

mención por su parte creo que hay cuestiones que impactan y afectan mucho en euskadi creo que

padres el subsidio para las personas desempleadas de más de cincuenta y dos años o que no haya dotación económica para el pacto contra la violencia machista y que ya no van a ser posible que es preocupante que la sociedad vasca no pueda beneficiarse de estas medidas que hay otros impactos también del adelanto

que estaban en tramitación en el congreso o a punto de llegar y que muchas personas en euskadi esperaban como puede ser la ley de eutanasia

la derogación de algunos aspectos de la ley mordaza o la reforma laboral del partido popular aspectos también para la igualdad ley de brecha salarial

intransferibles yo creo que a ustedes les preocupa dónde va a quedar el pnv el veintinueve de abril pero creo que sí que hay que comparar que a nosotros nos preocupa

confundido confuso no sé si me está hablando al partido nacionalista vasco al gobierno vasco qué

actitud hemos de tomar ante lo que pueda ser la acción en el congreso de los diputados y en el senado que corresponde a los partidos políticos

nuestra si estamos hablando de la legislatura española culminada si estamos hablando de la legislatura próxima y lo que corresponde a los partidos políticos

mientras se cierra y se reabre la legislatura en el estado señor martínez aquí tenemos una oportunidad para seguir avanzando yo soy consciente de que el fin temprano

de trabajo pendiente en todo caso yo me quedo con lo positivo que es que por primera vez tenemos un reconocimiento formal por parte de un gobierno español

incumplido algo con lo que no hemos contado desde que el parlamento aprobó en mil novecientos noventa y tres el primer informe de transferencias pendientes

tener su contrapunto con una mayor apertura

a los acuerdos este camino no es nuevo en las relaciones entre el gobierno vasco y elkarrekin podemos por mucho que se diga lo contrario tanto de nuestro gobierno insisto

desde el diálogo y el trabajo conjunto con resultados positivos en los casos por ejemplo de las leyes antidopaje patrimonio cultural o profesiones deportivas

o el plan de formación profesional ayer mismo también con la aprobación de la ley de sostenibilidad energética de la administración pública considero que mientras en el estado están a elecciones aquí podemos seguir trabajando por ejemplo la ley de empleo público la nueva ley de modificación de la ley para igualdad de hombres y mujeres y erradicación de la violencia machista contra las mujeres

o de la renta de garantía de ingresos o mejorando las políticas de ayudas a las familias la preocupación por las personas el gobierno vasco ha tendido la mano a todos los grupos también al suyo para conseguir y para seguir trabajando nuevos acuerdos eskerrik asko

gracias presidenta buenos días lehendakari señores consejeros señor arriola

en un modelo de economía circular como el que deseamos y al que aspiramos el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible

y los recursos se reintroducen repetidamente al ciclo productivo creando valor cuando los bienes llegan

para facilitar la transición hacia una economía más circular la comisión europea lanzó ya en diciembre de dos mil quince una serie de propuestas legislativas revisadas sobre residuos así como un completo plan de acción que establece un mandato concreto para la actual comisión en ese sentido las propuestas sobre residuos recogen una visión a largo plazo clara y ambiciosa sobre el aumento del reciclaje y la reducción de los vertidos y plantean al mismo tiempo

existentes en sectores o materiales específicos como los plásticos los residuos alimentarios las materias primas críticas la construcción y demolición la biomasa y los bioproductos

con el fin de poder valorar la importancia de la economía circular para euskadi podíamos dar datos que constatan la alta dependencia exterior de nuestra economía respecto a las materias primas

que reveló la puesta en marcha de soluciones innovadoras más circulares que supondrían un importante ahorro cuando hablamos de jerarquía de residuos la primera estrategia es la prevención pues bien consideramos que el ecodiseño es la principal herramienta en la prevención de generación de residuos y donde más oportunidades y beneficios encontramos para nuestras empresas vascas

los equipos eléctricos la máquina herramienta metal químico mobiliario edificación y el agroalimentario el camino recorrido en euskadi deberíamos reconocer que hasta la fecha es importante

para avanzar en este proceso de transición se identifica como fundamental la colaboración y relación entre todos los agentes de modo que la visión no sea únicamente la circularidad de las empresas

la competitividad el empleo y la sostenibilidad del territorio la economía circular debe conducir a una sociedad sostenible y mejor para nosotros y las generaciones futuras tal y como planteábamos en la justificación su departamento ha anunciado la elaboración para este año de una estrategia de economía circular para euskadi a diez años vista por ello le planteábamos la pregunta qué líneas de trabajo está llevando a cabo el departamento que usted lidera
para impulsar a economía circular en euskadi nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

para hacer sostenible nuestra economía cambiar el actual modelo lineal de extraer usar y tirar los recurso o el de reducir reutilizar y reciclar

sino también un buen negocio ambiental y social lo demuestran los datos que hemos obtenido en euskadi se puede crecer económicamente al tiempo que mejoramos las variables medioambientales y reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero estamos en una posición destacada

pero hay que avanzar involucrando a toda la sociedad y a todo el territorio en esta transición estamos ya dando un impulso definitivo

dos mil treinta que va fijar las metas y las actuaciones concretas para transformar nuestro modelo económico

que nos dice que estamos bien posicionados y que la aplicación del modelo puede mejorar significativamente

y el empleo como usted ha dicho se han identificado los sectores con mayor potencial y también las cinco líneas prioritarias el ecodiseño

el reciclado de residuos con metales claves y los plásticos y caucho

hemos desarrollado los indicadores de economía circular que nos permitirán testar la eficacia de las acciones marcadas en la estrategia y también

sobre la economía circular en relación a la competitividad y la gestión de los residuos

son mayores para los productos o negocios de economía circular que para los productos tradicionales de hecho las empresas vascas líderes

en productos de economía circular y aplicando medidas sencillas

del seis por ciento de las materias primas que consume lo que supondría

de euros duplicar la tasa de uso de material circular

con especial énfasis en los plásticos y los desperdicios alimentarios son objetivos de la estrategia además se ha redoblado la puesta en marcha de los instrumentos y herramientas públicas destinados a impulsar tanto la demanda de la economía circular como la oferta la primera mediante deducciones fiscales y subvenciones a la inversión en equipos las tasas al vertido

y el programa de compra pública verde gracias a este en dos mil dieciocho

en las licitaciones públicas en las administraciones vascas tres veces más que en dos mil diecisiete la oferta se estimula con programas de ayudas a la innovación para desarrollar iniciativas en ecodiseño ecoinnovación y proyectos demostración en economía circular

dos mil dieciséis y dos mil dieciocho han sido noventa y ocho los proyectos innovadores

seguiremos trabajando porque la economía circular no es únicamente convertir residuos en recursos es una transformación del submodelo económico que nos debe conducir a una sociedad sostenible mejor para nosotros

en su primera respuesta me ha parecido que usted parafraseaba a cánovas del castillo habrá sido sin querer

las libertades de los vascongados benefician a quienes las disfrutan

la justa envidia que en otros excitan yo quiero decir de entrada

a defender las libertades de los vascongados y es mi compromiso y lo voy a seguir haciendo siempre he hecho eso y ese es el compromiso también de nuestro grupo y que esas libertades de los vascongados dentro de una españa plural se traduzcan en

nuestro autogobierno nuestra foralidad nuestro concierto económico dentro de una españa integrada plural

eso es a lo que hemos dedicado todo nuestro esfuerzo político siempre y en lo que yo puedo colaborar con usted cierra una legislatura que ha tenido dos fases una primera fase de entendimiento donde había un gobierno dispuesto

esas señas de identidad de lo vasco en el conjunto nacional que se saldaron con importantes acuerdos acuerdos que son históricos y que ustedes los calificaron como tales

en el acuerdo de renovación del concierto económico y de la ley del cupo acuerdos históricos sobre inversiones fortalecimiento del papel de españa en el país vasco sacando adelante inversiones que han sido largamente postergadas y por tanto colaboración estabilidad entendimiento y su partido tomó una decisión yo no he venido aquí a hacerle reproches y tampoco le voy a decir que muestre su arrepentimiento por esa decisión

de que ustedes tienen que pensar que esa decisión fue errónea y que hemos hecho muy mal negocio porque la siguiente parte de la legislatura no la ha marcado esa búsqueda de entendimiento o de estabilidad o de fortalecimiento de las cosas que nos unen la han marcado los independentistas catalanes y hemos estado todos al albur de lo que decían o no decían los independentistas catalanes que es lo que habían puesto finalmente a pedro sánchez y usted

a pesar de las promesas que le hizo pedro sánchez y el gobierno que ustedes pusieron que puso su partido en madrid

nada más que palabras nada más que humo no ha habido nada perdieron también aquí la posibilidad de tener una mayoría que diera una estabilidad y permitiera trabajar

les bastaba firmales un papel a los de bildu para que les dieran el apoyo y tampoco esa es así porque el camino del soberanismo nunca conduce a la estabilidad

que el negocio ha sido doloroso y malo para todos para nosotros también y yo lo que le quiero decir hoy

y viene una nueva legislatura y se lo digo con sinceridad mire usted el futuro con confianza si se han equivocado en el pasado

no piense que los caminos son cerrados no crea que está usted abocado a hacer lo que le digan desde cataluña no crea que está usted abocado a apoyar una mayoría que solo conduce a la parálisis y piense ya sé que es difícil lo que le digo pero piénselo que el camino de colaboración de la rectificación y en la búsqueda nuevamente de la estabilidad siempre es posible siempre es posible si ustedes eligen

asociando nuestra suerte a lo que pase en cataluña ese camino no va a llevar a ninguna parte no piense

están los caminos cerrados piénselo despacio señor lehendakari porque lo que nosotros deseamos

que se ha vivido en los tres últimos años en la relación con los gobiernos españoles es similar a lo que haya podido ser la referencia a una emulación a cánovas del castillo desde luego pierda usted cuidado porque lo que yo he dicho es

usted me pregunta por la valoración de la legislatura que acaba de terminar benévolamente diré que la valoro como una legislatura breve y accidentada no menos revuelta que la anterior

un desbarajuste también que les afecta a ustedes señor alonso crónica del desbarajuste elecciones veinte de diciembre de dos mil quince imposible sesión de investidura

nuevas elecciones veintiséis de junio dos mil dieciséis meses de negociación rajoy presidente con los votos de pp ciudadanos coalición canaria foro asturias

abstención de la mayoría del partido socialista obrero español y voto en contra del partido nacionalista vasco señor alonso señora iriarte voto en contra del partido nacionalista vasco

y terremoto político primero ciudadanos retira su apoyo al gobierno del partido popular segundo ciudadanos unidos podemos acuerdan moción de censura para convocar elecciones en el próximo periodo de sesiones señor alonso esta es la realidad tercero el partido socialista obrero español presenta una moción de censura el uno de junio

fin a diez meses de gobierno accidentado valoración

padece un grave problema de inestabilidad aquejada de incomunicación política e incapacidad para el acuerdo el bipartidismo ha quedado atrás y no se ha demostrado capacidad para gestionar un hemiciclo más plural de la política española parece entretenerse en la demagogia y en trazo grueso en plantear grandes acusaciones y jugar a la búsqueda del culpable

usted viene insistiendo en que hemos hecho un mal negocio apoyando a pedro sánchez mire señor alonso el gobierno vasco no tiene voto en el congreso ni en el senado nuestra relación es institucional y la hemos ejercido para favorecer un clima de entendimiento y colaboración leal repito leal con el gobierno español y también con rajoy con rajoy logramos el acuerdo del concierto y el cupo o el acuerdo para finalizar el tren de alta velocidad en dos mil veintitrés sí luces

tampoco que dejaran de recurrir las leyes aprobadas por este parlamento ni tan siquiera conseguimos evitar que ustedes presentaran

a su propio presupuesto y tratar de perjudicar con ello los acuerdos positivos para euskadi señor alonso esta es la realidad luces sí muchas muchas señor alonso ayer asistimos a la sombra de las sombras en el senado anteayer se aprobó una moción presentada por un senador

instando al gobierno español a incumplir la legalidad vigente y hasta la propia constitución me parece un tremendo desatino es insólito defender que cumplir la ley

no es uniformidad no es uniformidad señor alonso un ejemplo felizmente superado la uniformidad que impuso el franquismo generó la mayor de las desigualdades

en marcha medidas que afectan a toda la ciudadanía sin embargo para tomar decisiones de calado solo se tienen en cuenta las necesidades demandas y los intereses de unos pocos las principales políticas y decisiones que se están poniendo en marcha en euskadi responden fundamentalmente a la influencia y a las propuestas de las élites económicas de las grandes empresas

y están al servicio de un sistema que es voraz con los derechos de todas y todos

y unas instituciones que pongan la vida digna de las personas en el centro de su organización porque creemos realmente que este es el único camino posible hacia una sociedad más justa

hace que gobiernos e instituciones tengan una visión patriarcal y fragmentada

imprescindible para sostener el desarrollo de un país hace unos días una de las figuras políticas más relevantes de este tiempo la alcaldesa de barcelona ada colau hacia una reflexión muy interesante sobre lo que algunos políticos llaman

utilizaba las palabras de un señor político catalán que tildaba de pequeña política el trabajo de ada colau que como todas sabemos está haciendo políticas avanzadas

la erradicación de las violencias machistas la regulación del alquiler para terminar con la especulación o la mejora del transporte público

ada colau en barcelona es sin duda una referencia de cómo hacer políticas que como dice ella son políticas para conquistar derechos

en derechos civiles igual que en derechos sociales sin jerarquías es decir política grande y nosotras hoy queremos hablar de una parte importantísima de la sociedad una parte que históricamente ha sido invisible para los ojos de la política tradicional

años está conquistando un hueco en la agenda política aunque para algunos como hemos visto se trata de política pequeña hablamos de los cuidados de la atención

de todas las tareas imprescindibles para sostener las vidas y la reproducción social y no hablamos de natalidad hablamos de reproducción cultural hablamos de educar de socializar de transmitir valores habilidades para la convivencia es decir todo eso que se dice que hacen las familias

y que en realidad durante siglos vienen haciéndolo sobre todo y ante todo las mujeres en la realidad cotidiana de las personas anónimas esas que no tienen tribunas ni pueden

han sido las mujeres anónimas e invisibles las que durante siglos

para sobrevivir y vivir con dignidad y que también necesita el sistema entero para mantenerse a flote todas las mujeres y todas esas tareas fuera de focos han sido y son ignoradas por quienes toman las decisiones y dirigen las instituciones

esa realidad cotidiana se coloque en el centro de las preocupaciones de las instituciones y de

la atención a las personas dependientes los niños niñas personas enfermas personas mayores o con diversidad funcional son una preocupación cotidiana para todas las familias

cuidados ese trabajo no reconocido y no remunerado mayoritariamente realizado por las mujeres de la familia ha empezado a salir a la luz como quien dice hace dos días

crítica feminista quienes han sacado los cuidados de la oscuridad y han demostrado que es una parte fundamental del andamio para la construcción del sistema económico que tenemos

porque la realidad es que ha profesiones que están ocupadas sobre todo por mujeres

y no es casualidad que habitualmente los sectores donde hay más mujeres tengan un reconocimiento simbólico menor pero también un reconocimiento material menor los salarios son más bajos y las condiciones laborales más precarias en comparación con los sectores masculinizados esto

no podemos hablar de acabar con la brecha salarial con el techo de cristal con el suelo pegajoso no se puede hablar de alcanzar la igualdad sin mencionar cómo vamos a cambiar nuestro modelo económico porque deja de lado el bienestar de las personas y el bien común porque promueve y se soporta sobre el trabajo

porque el sistema siempre da prioridad a lo que se considera productivo y lo digo con muchas comillas porque a estas alturas todas sabemos

solo lo que tiene valor monetario y punto y según estas teorías tradicionales que algunos siguen teniendo en cuenta para tomar decisiones y gobernar solo esto tiene valor para el desarrollo de un país no importa qué impacto tiene en la vida de las personas así que

por ejemplo también se considera productiva curioso verdad también son productivas actividades económicas que generan impactos ambientales irrecuperables en generaciones y sin embargo no se cuenta ni se reconocen las actividades para la sostenibilidad de la vida y la reproducción social

bruto del estado español la construcción aportó un diez coma seis por ciento

eso lo dice un estudio publicado recientemente por una plataforma de grandes empresas

de que las preocupaciones cotidianas de todas las familias y de las mujeres en especial

y la atención necesarias pasen a ser una preocupación de toda la sociedad

que busquen dar respuestas a necesidades inmediatas y también que busquen cambios más de fondo más profundos para no estar eternamente

lehendakari que le preguntamos qué van a hacer ustedes para avanzar

que sea más justa e igualitaria hacía una sociedad en la que todas y todos con el liderazgo de las instituciones nos hagamos responsables del cuidado y de la atención
de quienes lo necesitan besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana

y se encuentran laboralmente ocupadas en las mujeres recae la opción de solicitar y hacer uso de la reducción de jornada con la penalización de la trayectoria profesional

en régimen de doble presencia recae la opción de gestionar la derivación del cuidado del menor o menores hacia otras mujeres en algunos casos servicio doméstico

como son los familiares y también preferentemente las abuelas todo ello tiene una consecuencia una serie de dobles jornadas o de triples en las que las mujeres

inmersas y su penalización en el mercado laboral entre otros para el gobierno vasco constituye una prioridad que las personas puedan conciliar la vida personal

nos enfrentamos a obstáculos que lo impiden muchos de ellos estructurales como por ejemplo la diferencia salarial entre hombres y mujeres que provoca también que la elección

otro de los factores condicionantes es la lentitud de proceso en que los hombres se están implicando en la participación del trabajo doméstico

el gobierno vasco entiende que debemos avanzar hacia un cambio de paradigma a la hora de hablar de las necesidades de cuidados que precisa una sociedad avanzada como la nuestra ese cambio de paradigma viene ya recogido como objetivo y eje

situar la vida en el centro para que sea sostenible en términos de continuidad de calidad de vida

en el que vive el conjunto de la ciudadanía ese nuevo paradigma

de calidad y en el que las necesidades de cuidados estén atendidas sin que nadie tenga que renunciar para garantizar su previsión ni a sus ingresos

así el plan de igualdad tiene como uno de sus ejes estratégicos la transformación de las economías y la reorganización social para garantizar los derechos concretamente en el punto cinco

así como en las vías para apoyar la corresponsabilidad en su provisión tiene como objetivo en primer lugar reconocer socialmente los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida

visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados no remunerados y por último apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión

desde hace mucho tiempo desde el año dos mil cinco con una ley para la igualdad que regula una serie de medidas dirigidas a promover la igualdad real y efectiva

se considera como una de las áreas de prioridad e intervención la intervención ha de dirigirse a promover proponer y construir nuevos modelos de relación entre mujeres y hombres

y por supuesto ha de procurar una transformación profunda y estructural de los valores sociales sobre los que se sustenta esta división sexual del trabajo y del mundo

en primer lugar y en cuanto a la corresponsabilidad en la ley de empleo público vasco se ha impulsado el establecimiento de disposiciones relativas a los permisos por motivos de conciliación de la vida

entre otras contempla un permiso de reparentalidad de dieciséis semanas para cada integrante de la pareja con remuneración del cien por ciento de la base de cotización y con carácter intransferible

y con campañas para la implicación de los padres en las tareas de cuidado de hijos e hijas de forma corresponsable por otro lado también

organizacional que traiga consigo una mayor flexibilización de horarios entre otras medidas y en este sentido ofrecemos ayudas a través de emakunde a las empresas para que realicen diagnósticos y planes de igualdad en su seno contamos ya con un centenar de empresas colaboradoras en igualdad y creamos una red de empresas como bai sarea comprometidas

de distintos sectores ya están participando en esta iniciativa

y esperamos que cada año se sumen más a esta dinámica esta experiencia tendrá su continuación en nuevas medidas para incorporar planes de conciliación en las empresas

un asesoramiento acerca de las virtudes que ofrece para tanto las empresas como para los trabajadores la implementación de medidas tendentes a una corresponsabilidad en la conciliación

y nos hemos propuesto como gobierno que las tareas de cuidados presentes o futuros

queremos evitar la pregunta que en muchas entrevistas laborales se realiza únicamente a las mujeres jóvenes piensas tener hijos otra medida

que vamos a poner en marcha va más allá y avanzamos en la tramitación de ese nuevo decreto que signifique un importante actual que ya tenemos con el objetivo de mejorar las ayudas a la conciliación queremos que nos permita por un lado introducir una prestación económica

de las excedencias para el progenitor no gestante hasta las dieciséis semanas así se iguala dicho periodo al del actual permiso de maternidad a disfrutar en los doce meses posteriores al nacimiento y en un periodo distinto al del permiso de maternidad con una cuantía equivalente al cien por ciento de la base de cotización y esta medida

es pionera en el estado y está por encima de los estándares recomendados recientemente por las instituciones europeas eremu horretan ezin dugu ahaztu

para hacer frente a la discriminación salarial en el país vasco donde las mujeres

para solucionarlo han de implicarse todos los agentes sociedad empresas e instituciones

que las personas concilien su vida personal familiar laboral y que lo hagan en igualdad así lo estamos definiendo con nuestro planes iniciativas y medidas y nuestro trabajo es referencia para otras comunidades y países interesados

bai eskerrik asko señor urkullu por la respuesta tenemos un modelo de atención a la dependencia señora artolazabal que está basado en el esfuerzo de las familias bueno perdón de las mujeres sobre todo de las mujeres adultas

laboral para que se queden a cuidar en sus casas y que además ni funcionan ni son adecuadas ni tan siquiera se cuestionan el porqué de que

siga sin gastarse usted se basa en un modelo de atención patriarcal

en una sociedad que gira alrededor de otros intereses por eso miles de familias están siempre corriendo para llegar a todo sin poder llegar a tiempo a nada

que no garantizan los derechos de las mujeres que no promueven la igualdad y que pone en riesgo el derecho de los cuidados en definitiva que está muy lejos de los países nórdicos que tanto les gusta a ustedes mencionar fíjese a las mujeres con este modelo se les exige responder en el empleo como si no tuvieran que cuidar

es decir están exigidas y exprimidas por todos lados

estas políticas que usted ha mencionado que dicen que habría que hacer

no existen eso sí en el papel queda súper chulo no hay más que mirar sus presupuestos

o los servicios que ustedes brindan a la ciudadanía para darse cuenta que la atención de las situaciones de dependencia a las situaciones de igualdad

no está entre sus prioridades son un montón de satélites sus planes en un universo que les importa poco pero eso sí

son verdaderas estrellas ustedes no cambian ni transforman absolutamente nada eso sí secuestran a cualquiera porque como nos roban el lenguaje

nosotros lo tenemos claro hablamos y proponemos avanzar hacia una organización social

horizonte conseguir vida digna de todas las personas de todas no de unas sobre otras señora artolazabal un modelo de desarrollo sostenible justo y que sea para todas y para todos un modelo que garantice el derecho a los cuidados a todas las personas que brinde a las mujeres la oportunidad de elegir si quieren cuidar o no y no se las obligue que sus planes eso es lo que promueven y que ellas mismas tengan asegurado el derecho a ser cuidadas de forma digna para iniciar ese camino

para empezar hay que querer hay que tener voluntad hay que dejar de lado una forma de hacer política que tradicionalmente

y menospreciado todo lo que es imprescindible para la sostenibilidad de la vida y la reproducción social porque señoras y señores no hay sistema

sin tener en cuenta los cuidados en todas sus dimensiones y el trabajo que recae sobre las espaldas de las mujeres

generoso público abierto y plural y sobre todo que haga

y en ese debate señora artolazabal se debe comprometer a toda la administración pública a toda la empresa privada a los agentes sociales y económicos al tercer sector

y además de un debate profundo hay que revisar lo que se tenga que revisar sin miedo reconducir lo que no está bien eso sería una demostración de responsabilidad por su parte

las ayudas a la conciliación hay que revisarlas lo antes posible y el sistema de atención a la dependencia también

una respuesta publica universal integral e integrada

no está haciendo porque está ocupado en planes y medidas parciales señora artolazabal que no está resolviendo ni respondiendo a los grandes desafíos que se presentan en este tiempo mire póngase las pilas y déjenos de grandes titulares que solo son eso titulares

no existen o no se las esperan o son perversas

yo señora arana cuando hablamos de estas cuestiones y de otras muchas me suelo a veces

parece ser que ustedes son los únicos que tienen la potestad

en este caso de las mujeres a la hora de poder llevar adelante iniciativas que para ustedes las nuestras son patriarcales que las nuestras las que este gobierno

solo hacemos iniciativas que en ningún sitio y en ningún momento redundan en nada pero siempre vienen a vernos para copiarnos

por qué no reconoce que las cosas no se están haciendo bien yo no le voy decir que las cosas todas se estén haciendo bien

en conjunto todo este gobierno y este parlamento y esta sociedad están haciendo bien haciendo una apuesta decidida por la lucha contra la brecha salarial haciendo una lucha decidida por las ayudas haciendo una lucha decidida por las familias tenemos ese cuarto plan de familias que sí que aparecen medidas concretas con presupuesto concreto que aparecen en los presupuestos y en la prórroga de presupuestos que ustedes no quisieron saber nada

como algo importante a la hora de trabajar en el ámbito de la corresponsabilidad y en el ámbito de la conciliación y nosotros que ponemos dieciséis semanas

de las instituciones vascas sino también para los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas

tenemos muchas cosas que mejorar pero desde luego también hemos hecho muchas cosas y las hemos hecho entre todos en este decreto que estamos modificando tenemos en cuenta las necesidades de los diferentes tipos de familias

para que puedan ayudar a la conciliación y a la corresponsabilidad

también se ha puesto una medida de servicios que no tiene que andar la gente

hay una apuesta de este gobierno con la gratuidad de las haurreskolas que fue debatido

hicimos en el que este gobierno dentro de las iniciativas que los grupos presentaron y que nos parecieron iniciativas acordes para seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres dijimos que las rentas menores de dieciocho mil euros

ya está puesta en marcha una iniciativa puesta en marcha señora arana

tenemos una mirada dirigida a europa cuando diseñamos la planificación estratégica y en ese sentido la comisión europea propuso en abril del diecisiete la iniciativa conciliación de la vida familiar y de la vida profesional que era uno de los objetivos y es el pilar europeo de derechos sociales

un acuerdo provisional para trabajar en el ámbito de las ayudas y de la conciliación en virtud de esa

a cuatro meses de permiso parental estableciendo que dos meses no sean transferibles entre los progenitores e introduciendo una compensación para estos dos meses

y en euskadi hablamos de compensación económica equivalente al cien por ciento de la base reguladora para el progenitor no gestante que permitirá igualar el permiso

en el ámbito público y en el ámbito privado es importante seguir trabajando para facilitar la conciliación de la vida laboral personal y familiar

la igualdad no es una cuestión de derechos humanos es además un factor fundamental para el buen gobierno y para el desarrollo humano social y económico de los pueblos y esto no es una mera afirmación retórica sino que es una realidad avalada por los datos señora arana

pero también hemos hecho mucho trabajo y entre todos tenemos que avanzar señora arana y espero sus propuestas propuestas concretas que mejoren la igualdad entre hombres y mujeres que en esta sociedad llevamos tiempo hace mucho tiempo trabajando mila

lehendakari jauna como bien sabe en euskadi la brecha salarial es del catorce coma trece por ciento si se toma como referencia el indicador europeo de ganancia por hora pero la desigualdad se agranda al comparar la ganancia media anual ya que un hombre vasco gana treinta y uno mil euros frente a los veintitrés mil de una mujer lo que supone

es decir un veinticuatro coma cuatro por ciento la brecha salarial es la manifestación en términos retributivos

y refleja la discriminación y desigualdades que afectan a las mujeres en el mercado laboral

es un hecho por tanto que la brecha salarial en euskadi es evidente y que las mujeres cobramos menos que los hombres

es uno de los temas centrales de la agenda política de nuestro grupo parlamentario y venimos trabajando para impulsar diferentes medidas que puedan contribuir a eliminar la brecha salarial hace un año en febrero de dos mil dieciocho a iniciativa de elkarrekin podemos se alcanzó un acuerdo por unanimidad en el parlamento vasco para intervenir sobre la brecha salarial en este acuerdo instábamos al gobierno vasco a presentar un plan de acción para que en el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte se reforzaran las políticas del departamento de trabajo y justicia

para la eliminación de la brecha salarial a promover también junto a las agentes sociales un debate en profundidad y a elaborar medidas que formen parte de un plan de acción además

con el fin de informar y animar a las mujeres trabajadoras a denunciar los casos de desigualdad retributiva

el congreso votaba a favor de una proposición de ley presentada por unidos podemos para la igualdad salarial

la igualdad salarial como es hoy el gobierno vasco anunció a bombo y platillo que se constituía una mesa para abordar la brecha salarial hay que señalar que dicha mesa hasta la fecha ha realizado dos reuniones

por lo que las reuniones no tuvieron resultados reseñables en relación con la brecha salarial hay que recordar

llegó a un acuerdo con confebask a espaldas de los sindicatos y del espacio de diálogo entre agentes es por ello que los sindicatos en su totalidad

incluida la mesa para abordar la brecha salarial por consiguiente la representación de las trabajadoras en esta estrategia ha tenido una participación

y en un contexto en el que el diálogo entre los agentes estuvo roto debido a las actuaciones del gobierno vasco

se continuó con la elaboración de un borrador de una estrategia y se realizaron una serie de jornadas en las tres capitales invitando a diferentes

sorprendentemente en el listado de las organizaciones convocadas y entre las que finalmente participaron nos sorprende la presencia de organizaciones feministas que fue casi

el gobierno vasco insiste en impulsar políticas para la igualdad sin contar con la participación real de los agentes sociales

así que tenemos un estupendo documento sobre brecha salarial sin el respaldo de sindicatos y trabajadoras y sin la perspectiva de las mujeres organizadas en el movimiento feminista a todas luces un grave error señor urkullu porque ustedes han presentado una estrategia

un plan operativo con cuatro ejes veinte directrices y sesenta medidas que quedan muy bien sobre el papel

le voy a explicar alguna de sus incoherencias en la plantilla del gobierno vasco se constata una brecha salarial de un ocho coma cinco por ciento este también es un dato que han facilitado ustedes mismos no hemos visto en la estrategia que presentaron ni una sola acción clara que represente el compromiso sin fisuras del gobierno

en su propia casa otra cuestión el gobierno vasco da unas ayudas para la conciliación que promueven que las mujeres dejen el mercado laboral y se dediquen a cuidar en su casa a hijos e hijas o familiares dependientes es una irresponsabilidad y una incoherencia total afirmar en el discurso

social de los cuidados y al mismo tiempo poner medidas concretas y recursos concretos que promueven la salida del mercado laboral y profundizan en la brecha salarial todos estos elementos son suficientes para que pongamos en duda las posibilidades de que esta estrategia

más otro recurso más para ponerse medallas y no cambiar ni solucionar absolutamente nada en general desde elkarrekin podemos ponemos entre muchos interrogantes todos los anuncios

relativos a igualdad o violencias machistas es evidente señor lehendakari

ni en el debate que se da en el marco de la mesa de brecha salarial

referencias a análisis y acciones para eliminar la brecha salarial en sus ámbitos de responsabilidad como garante de la aplicación de esta política en las administraciones públicas no hay análisis ni acciones en la subcontratación de las administraciones públicas ni en las fijadas

públicas todo ello no solo es motivo de incoherencia hacer un plan general que no se aplica a los ámbitos propios de responsabilidad es un olvido cuanto menos curioso cuando no absolutamente premeditado lo que se demuestra es que no se predica con el ejemplo haz lo que yo diga pero no hagas lo que yo hago la doble moral de las administraciones públicas

mientras en el día a día dan la espalda a las mujeres que sufren una inaceptable brecha salarial el gobierno vasco y usted como lehendakari

de no tener un plan completo pues entre otras ausencias o deficiencias no incluye el ámbito de la responsabilidad como empleadora indirecta de las administraciones públicas vascas y ni tan solo tiene una estrategia concreta en relación al empleo externalizado utilizando las cláusulas sociales por ejemplo

en los ámbitos de gestión propios o en general de las administraciones públicas vascas sin embargo se dice

que en el plan se van a establecer cláusulas sociales para la priorización de las empresas

se hace todo lo contrario se opone a ella y la combate para evitar que salga adelante negando por ejemplo la introducción de cláusulas sociales

de ejecución para la igualdad retributiva en la contratación pública en la actualidad señor urkullu existen en euskadi diferentes conflictos laborales

afectadas por la brecha salarial y ante la que su gobierno desde la coordinación interdepartamental y la voluntad política podría ayudar a resolver uno de los más paradigmáticos por el cual ya le pregunté en el último pleno de control del dos mil dieciocho que es el conflicto laboral

de la limpieza de oficinas judiciales y comisarías de gipuzkoa a día de hoy continúan en huelga indefinida

en la ampliación constante de servicios mínimos y recientemente

claramente vulneratorio del derecho de huelga tenemos también

de las residencias y centros de día en gipuzkoa que por el momento han realizado dieciocho jornadas de huelga en el dos mil dieciocho y ya han comenzado con la huelga del dos mil diecinueve

ayuda a domicilio de bizkaia donde tienen unas condiciones precarias y tanto las patronales prestatarias de servicios como los ayuntamientos titulares del mismo

son dos de los ejemplos que también y le podríamos dar más de los casos abiertos que usted tiene con respecto a la brecha salarial estos casos

ante los que las instituciones han mostrado su postura de oposición y bloqueo hasta el final por ejemplo las residencias de bizkaia para el convenio colectivo

tenemos también la huelga de comedores escolares de gestión directa en el sector de edificios y locales de las subcontratas de ámbito público se han dado pasos hacia la equiparación salarial el convenio de limpieza de la diputación de gipuzkoa el convenio sectorial de limpieza y oficinas y locales

de donostia a pesar de la oposición de resistencia de las distintas administraciones públicas se consiguen acuerdos en el ámbito

hay que reconocer que no lo hacen porque haya una posición proactiva de su gobierno y se avanza en la reducción de la brecha salarial pero no porque ustedes

sino por la voluntad de las trabajadoras tienen ustedes señor lehendakari una oportunidad muy buena y muy clara de actuar y de luchar

solucionando estos conflictos y haciendo efectivas y real la lucha contra la desigualdad

siento que no esté presente en el salón de plenos la interpelante del punto anterior pero permítaseme comenzar esta intervención

defendidas aquí en tribuna por personas diferentes a las que firman las mismas por escrito delegue también

a cuestiones concretas en las consejeras y consejeros del gobierno que por mayor concreción porque son ellas y ellos quienes gestionan los temas por los que se me preguntan

en todo caso creo que las respuestas que ofrecemos los miembros las del gobierno vasco son en todo caso siempre respetuosas

el pasado catorce de diciembre con motivo de una pregunta relativa a la brecha salarial en el sector de limpieza las medidas que este gobierno ha puesto en marcha para reducir la brecha salarial abordan tres ámbitos inspección mediación y respuesta estructural

de evitar confundir a la opinión pública señora garcía a veces utilizamos los términos de discriminación salarial y de brecha salarial de forma equivalente y no es lo mismo la discriminación salarial se da cuanto en una empresa se paga de forma distinta una mujer que realiza trabajos de igual valor que un hombre

ilegal y denunciable ante los juzgados y la inspección de trabajo cuando hablamos de brecha salarial de género nos referimos a la diferencia entre lo que cobran de media hombres y mujeres tomados como colectivo de forma global la brecha salarial

un menor salario bruto por hora trabajada como consecuencia de que las mujeres ocupan categorías laborales menos valoradas económicamente y por otro lado

mayores índices de parcialidad y de temporalidad en sus contratos de trabajo la brecha salarial señora garcía es por lo tanto un problema complejo de carácter estructural

también y sobre todo factores socioculturales

y un menor número de horas dedicadas al trabajo retribuido por parte de las mujeres dicho esto señora garcía nuestro compromiso

en el entorno laboral es claro el programa de gobierno establece de manera explícita el compromiso de combatir la discriminación salarial e impulsar

compromiso diez del programa de gobierno también impulsar medidas económicas y sociales para avanzar en la igualdad retributiva promover la transparencia salarial en las empresas y combatir la discriminación salarial compromiso ciento cuarenta y seis del mismo programa de gobierno en consecuencia con estos compromisos

el consejo de gobierno aprobó la estrategia y plan operativo de acción

cuya meta es que euskadi se sitúe entre los países europeos con menor desigualdad salarial somos conscientes de que las consecuencias de esta desigualdad salarial

mayores índices de pobreza y una incidencia directa en las cotizaciones a la seguridad social y en consecuencia también a las pensiones sabemos que la discriminación salarial

por un trabajo de igual valor es poco frecuente y sería ilegal ahora bien sabemos que las normas contra la discriminación salarial por razón de sexo más eficaces a la hora de garantizar la igualdad retributiva por un trabajo de igual valor esto quiere decir que hay trabajos a los que corresponde un conjunto equivalente de requerimientos y que en consecuencia deberían garantizar un mismo salario estos requerimientos pueden

a igualdad de capacidades conocimiento aptitud e iniciativa igualdad de esfuerzo físico mental y emocional

o igualdad de condiciones de trabajo en todos los casos debe de evitarse incurrir en discriminaciones indirectas

egun hori ospatzen dugu estas cuatro medidas señora garcía responden a los compromisos recogidos en nuestro programa y dan un paso más en la igualdad efectiva uno estrategia y plan operativo de acción para reducir la brecha salarial en euskadi aprobada en el consejo de gobierno del veintisiete de noviembre sesenta medidas concretas y más de doscientos ochenta millónes de euros distribuidos en cuatro ejes de actuación reducir la desigualdad del salario hora

y potenciar las sensibilización y el compromiso empresarial y sindical dos mesa interdepartamental contra la brecha salarial constituida el veintinueve de enero

están representados los departamentos de empleo y política sociales trabajo y justicia

desarrollo económico e infraestructuras hacienda y economía y educación tres grupo específico de trabajo en la mesa de diálogo social encargado de avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales

este grupo de trabajo para abordar con organizaciones sindicales y empresariales organizaciones sindicales y empresariales medidas concretas dirigidas al fomento de la conciliación corresponsable el impulso e implantación de los planes de igualdad en las empresas y el tratamiento de la igualdad de género y de fomento de la igualdad retributivas

y cuatro el consejo de gobierno el pasado diecinueve de febrero todavía antes de ayer el pasado diecinueve de febrero aprobó una declaración institucional en favor de la igualdad salarial con motivo del día europeo por la igualdad salarial y mujeres este día se celebra precisamente hoy de febrero señora garcía estamos comprometidos y estamos ocupados estamos actuando en sentar las bases para conseguir

la brecha salarial y se posicione como uno de los países con menor

eskerrik asko bien admiro señor urkullu su capacidad de leer enumerando compromisos y medidas pero ahora

que es de lo que entiendo hemos venido a hablar usted me ha comentado y ha mencionado que

ha incorporado como novedad este año unidades especializadas en los tres territorios y que dirigidas

y la desigualdad de género en el ámbito laboral que es una de las medidas que se presentaron hace unos días

de trabajo la señora san josé sin embargo el presupuesto para combatir ese fraude en la contratación no llega ni a la

y tampoco resulta creíble el supuesto plan de choque que costará

estas cantidades son claramente insuficientes para incrementar los recursos humanos necesarios para hacer al fraude entendemos además que usted habla de la inspección de trabajo y

pero no es suficiente y además no hay como le he dicho suficiente dotación presupuestaria

nos parece completamente ridícula habla del plan enumera además le vuelvo a reiterar

la cual admiro profundamente pero es que hay una falta de concreción absoluta

a las cláusulas sociales y la teoría es muy bonita pero no todo se soporta en los papeles

de compromisos y de medidas que es evidente que no están solucionando

en la calle además hay una cuestión sobre la que usted no ha hecho ninguna referencia que son los casos de su competencia directa en donde me pregunto

en estos procesos además nos gustaría saber qué tares concretas y sobre qué ámbitos contratos convenios o sectores van a intervenir si van a intervenir en el empleo subcontratado por las administraciones públicas de forma prioritaria

en aquellos conflictos que les afectan directamente el caso

y comisarías es a todas luces evidente y además entendemos que en general no existe una voluntad política no existe una voluntad política de eliminar la brecha salarial

ante la patronal con sus actuaciones no solo con sus palabras los compromisos requieren actuaciones e intervenciones para promover en la negociación colectiva y sus ámbitos de competencia tres posicionamientos una subida fuerte del salario mínimo

mensuales entendemos que no es ninguna cifra caprichosa

que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por la crisis y que las rentas salariales recuperen peso y ganen terreno a la producción de riqueza

los bajos salarios se concentran siempre en sectores feminizados y todo ello aplicarlo también

son mayoría en un gran número de sectores subcontratados ya que los puestos de trabajo de las mujeres se consideran aún de menor valor más fáciles de privatizar y externalizar y hay que acabar con esta discriminación salarial de las mujeres en estos ámbitos podíamos promover una serie de medidas que su gobierno no aplica el próximo ocho de marzo las mujeres volverán a salir a las calles de forma masiva

y las mujeres reclamamos todos y cada uno de los días en el ámbito laboral desde hace décadas empleo digno basta de precariedad de privatizaciones de subcontratación y medidas efectivas para luchar
contra la brecha salarial eskerrik asko eskerrik asko

espero que siga usted admirándome por lo que puedan ser las acciones de este gobierno ya que tenemos una hoja de ruta y vamos a continuar nuestro camino para reducir la brecha salarial en todo caso me gustan estos discursos den elkarrekin podemos en los que siempre es ustedes ustedes ustedes ustedes ustedes y no hay nunca un nosotros nosotros nosotros nosotros y en nosotros nosotros me refiero a nosotros como partido al que hacía referencia algún parlamentario de entre su grupo

con el gobierno vasco y en este sentido también en relación a las propuestas que usted plantea o a las quejas o denuncias que usted plantea dónde quedó la voluntad negociadora de elkarrekin podemos en los presupuestos

en diciembre del año pasado mire insisto en que espero que tenga usted

porque reitero que el compromiso del gobierno es firme y estos son los próximos pasos concretos que vamos a dar este primer trimestre señora garcía uno plan específico de inspección de trabajo de igualdad retributiva el departamento de trabajo y justicia presentó este miércoles un plan específico de inspección de trabajo de igualdad retributiva

en dos de las principales causas generadoras de la brecha salarial la discriminación salarial y el fraude laboral señora garcía y dicho plan incluye la creación de unidades específicas e inspección en los tres territorios así como su formación en aspectos explicativos de la brecha salarial este plan intensificará las campañas de inspección de los planes de igualdad y se revisarán

de los planes de igualdad de las empresas este mismo año señora garcía dos elaboración de un estudio que delimite el concepto de trabajo de igual valor para garantizar el principio de igualdad retributiva

por trabajo de igual valor igual retribución por trabajo de igual valor este principio se contempla en los tratados europeos y

debe garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor tres adaptación del buzón virtual de lucha contra el fraude laboral se está procediendo

para facilitar la denuncia de situaciones de discriminación

y en este sentido en esta línea vamos también a incentivar desde la contratación pública desde la contratación pública medidas que contribuyan a reducir la brecha salarial el gobierno vasco va a aprobar próximamente

me refiero a la actualización de la guía para la incorporación de la perspectiva de género en los contratos públicos las subvenciones públicas los conciertos y los convenios sociales esta guía en fase de elaboración incorpora una descripción

con las condiciones laborales a favor de la igualdad en segundo lugar me refiero a la aprobación de una instrucción específica para la incorporación de cláusulas

y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública esta instrucción a los órganos de contratación de la administración general la administración institucional y entidades del sector público ofrece orientaciones sobre criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que se pueden incorporar en los pliegos para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres beraz laburbilduz

estas son las medidas que tenemos en marcha para abordar esta problemática reitero nuestro compromiso con la igualdad retributiva sabemos que el presente y el futuro de este país se fomentará en la igualdad de mujeres y hombres

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak hoy lehendakari le pregunto sobre un asunto de gran relevancia y que usted no en pocas ocasiones ha tratado en sus numerosas comparecencias públicas como es el tema de la violencia de género

lamentablemente de un compromiso incumplido el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete el gobierno

en el mismo se compromete a remitir el proyecto de ley de erradicación

antes de finalizar el año dos mil dieciocho al finalizar este año el año dos mil dieciocho no hemos tenido noticia de la aprobación de este proyecto de ley

ya sé señor lehendakari porque es algo previsible y eso a veces es bueno

y que se aprobó el decreto dieciséis barra dos mil dieciocho de diecinueve de octubre por el que se ordenó el inicio del procedimiento de elaboración de este anteproyecto de ley pero tengo que decirle que como usted comprenderá llega un poco tarde tampoco tenemos

de la violencia de género eskerrik asko

como bien sabe le diré que emakunde está trabajando para dar una respuesta al reto marcado por este gobierno y este parlamento reforzar la prevención y la respuesta frente a la violencia contra las mujeres

una nueva propuesta normativa a la que usted ha hecho referencia yo creo que la directora de emakunde dio cuenta de la situación y de los avances realizados en la comisión de igualdad de derechos humanos y de cooperación
de este parlamento por lo tanto a ello me remito por el momento eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lo que quiera señor lehendakari pero un compromiso claramente incumplido como tantos otros mire usted señalaba en su

que mientras en el estado están en elecciones ustedes están trabajando dos cosas le quiero decir respecto a esta afirmación

que ustedes no querían que ustedes no han querido porque preferían un gobierno débil agónico a un gobierno estable como el de mariano rajoy y luego todo el día pregonando estabilidad esa estabilidad que a usted últimamente se le está cayendo

esa estabilidad que tampoco tiene aquí y que le lleva a tener

que no tenía en un principio sobre la marcha para sacar por los pelos

de contenido presupuestario porque también hay que recordar señor lehendakari que usted ha sido incapaz de aprobar los presupuestos para el ejercicio dos mil diecinueve y a los hechos me remito señor lehendakari no estamos hablando de ciencia ficción

cuatro aprobados no contamos obviamente los presupuestarios y tampoco las últimas leyes aprobadas siete en tramitación es decir once ni la mitad siquiera once porque son solo cuatro aprobados y siete en tramitación de los veintiocho

un gobierno con problemas de verdad señor lehendakari departamentos y consejeros absolutamente cuestionados señor lehendakari educación

en donde usted tiene los peores resultados comparativamente con el resto de españa cuando usted tiene el mayor gasto por alumno

la red concertada que se lleva el cincuenta por ciento de los alumnos vascos qué me va a decir de la ope
del escándalo de la ope que ya esta semana hemos conocido que la genero biolentziari

la incapacidad de este gobierno y los problemas que este gobierno tiene que no vale mirar tanto para españa sino que este lehendakari se tiene que dedicar a resolver los problemas que tiene en el país vasco

con escándalos todos los días en los periódicos por no decir también en la materia de empleo y lanbide señor consejero

dónde está la reforma de las ayudas sociales dónde están las ayudas a las familias a las que usted se compromete
con dos años de antelación y no llega por su propia incapacidad eskerrik asko garrido anderea lehendakari jauna zurea da hitza

señora garrido creo que en la sesión de hoy hasta el momento por lo menos ha quedado evidenciado que son ustedes los que están mirando permanentemente a españa y no aquí a euskadi mire

y la relación con el gobierno vasco con respecto a la reforma de la renta de garantía de ingresos porque soy yo protagonista principal también en junio del año pasado su grupo parlamentario me solicitó que no se debatiera como otro grupo parlamentario también me le solicitó

en el pleno cuando estaba previsto y ustedes ayer han planteado retrasarlo hasta después de las elecciones municipales señora garrido ustedes han planteado retrasar la reflexión sobre la reforma de la renta de garantía de ingresos

mire el nueve de enero finalizó el proceso de trabajo de evaluación de los estándares de calidad en la atención a mujeres víctimas de violencia un trabajo que hemos realizado en colaboración con varias agencias de naciones unidas y ha servido para identificar los principales retos de futuro

ha sido el necesario para realizar un trabajo de calidad

ha permitido mejorar la nueva propuesta normativa que se presentará en el consejo de dirección de emakunde el próximo seis de marzo y espero que la representación que le corresponda

la normativa internacional de derechos humanos y el convenio de estambul del consejo de europa instan a los poderes públicos a legislar sobre violencia contra las mujeres y hacerlo reafirmando el vínculo existente entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres y este esfuerzo

para identificar cuál es la mejor propuesta normativa

euskadi fue pionera en este enfoque y desde dos mil cinco disponemos de una ley que dedica un capítulo específico a regular medidas tanto para la investigación prevención y formación como para la atención y protección de las víctimas reafirmando así el vínculo existente entre la discriminación de las mujeres y la violencia contra las mujeres somos conscientes de las obligaciones derivadas de la nueva normativa europea y estatal y por ello hemos estado trabajando

un refuerzo y ampliación de nuestra normativa y usted sabe bien señora garrido que hemos planteado lo que pudiera ser una alternativa a una nueva ley o una alternativa a lo que es la modificación de la ley vinculándolo con la igualdad y desigualdad entre hombre

contamos con cimientos sólidos contamos con marco legal con red de recursos de atención con mecanismos estables de coordinación con experiencia en diseño e implantación de planes de igualdad

en el trabajo preventivo y sobre estos cimientos el anteproyecto de ley actualmente en elaboración supondrá un paso más y reforzará las medidas desarrolladas tanto en la prevención y atención ante la violencia contra las mujeres

arretarako zerbitzuari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta
miembros del gobierno señorías buenos días a todos señor erkoreka hace dos semanas me sorprendió muchísimo al ver la nota de prensa que facilitan ustedes después de las reuniones del consejo de gobierno de los martes encontrar un informe estadístico del servicio de atención ciudadana de zuzenean y dije yo caray si estas es de las cuestiones relevantes políticas que

pero como usted no da nunca puntadas sin hilo dije me voy a leer el informe para ver qué es lo que encuentro y me encontré un dato por el que le doy la enhorabuena muy sorprendente que es que de la ochocientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y ocho cuestiones que se habían planteado a lo largo del año el noventa y cinco por ciento de los que habían acudido al servicio zuzenean

del servicio que habían obtenido en las consultas planteadas o en los trámites que habían iniciado

consultas en conjunto realizadas se habían llevado a cabo en euskera el dos coma seis por ciento en diversos idiomas y el resto

las que se han hecho en oficinas en las tres oficinas de zuzenean el diez por ciento se hacen en euskera el resto en castellano y entonces esos cientos

a los funcionarios igual resulta que no han servido de nada porque no pueden prestar el servicio en euskera adecuadamente

no puede ser porque ellos sí tienen la capacidad de trabajar de forma

la necesidad la obligatoriedad de que todos nuestros alumnos desde hace más de treinta años estudien el euskera o estudien en euskera íntegramente sirve para qué para que solamente el diez por ciento de la población demande esos servicios en euskera y quizá el señor erkoreka

y esa es mi pregunta de hoy considera que esa evolución porque además es negativa no solamente era un doce coma nueve por ciento sino que el año anterior era el catorce coma cuatro vamos bajando en el interés de los ciudadanos por dirigirse a la administración

nos va a anunciar un cambio de política está satisfecho con el resultado obtenido después de miles

dice usted esta es mi pregunta perdone no esa no es su pregunta ya veo que hoy el partido popular está por preguntas chistera de las que salen conejos

yo le voy a responder a la pregunta que usted ha formulado no tengo ningún inconveniente si usted quiere hablar del euskera y las políticas de normalización del uso del euskera en la administración pública de responderle

efectivamente en ese punto ese día en ese consejo de gobierno además de este asunto había

de los que se dio cuenta oportuna también en la rueda de prensa posterior dicho esto la valoración con respecto a las estadísticas y a la información resulta es positiva no es una valoración subjetiva de este consejero es decir que son informes de datos objetivos que resultan del estudio de análisis que se ha hecho del servicio objetivamente la satisfacción es plena la satisfacción ha pasado puesto que habla usted de estadísticas y de evolución de la estadística ha pasado en los años en los que

de una satisfacción del siete coma nueve por ciento a un ocho coma siete por ciento yo creo que la evolución es positiva es razonable en los tres

y la valoración es positiva también por lo que respecta a todos los aspectos que son objeto de evaluación el personal

la organización del servicio y la calidad de la información que se presta yo creo que esto es incontestable es innegable y no voy a profundizar más

básicamente a llevar a cabo gestiones o a recabar información

a partir de ahí perdone estamos hablando de un servicio de atención al público donde especialmente intensa hay que ser escrupuloso a la hora de diseñar la presencia de personal capacitado para prestar servicio en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma no estamos hablando de una unidad que está integrada en la estructura de administración y que jamás tiene ningún contacto con la administración sino de un servicio concebido y diseñado expresamente para relacionarse con la administración pública que entre otros debe cumplir

relacionarse con la administración pública en la lengua que libremente elijan muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

señor erkoreka yo le he preguntado por la evolución de la estadística en ese punto concreto en la relación entre los ciudadanos y la administración

de las cuestiones planteadas en euskera frente al castellano por los ciudadanos nada más

señor erkoreka y creo que lo que le traslado es precisamente a raíz de los datos que usted me facilita qué es lo que pasa con la evolución

por este asunto de los doscientos once mil documentos que se tramitaron en castellano en la diputación foral de álava en el ejercicio dieciocho las estadísticas del gobierno vasco no las tengo todavía y por eso

mil fueron en euskera dos mil quinientos bilingües doscientos once mil en castellano de todas las declaraciones de renta planteadas

están planteadas en euskara el noventa y nueve por ciento en castellano esa es la realidad sociolingüística

señor erkoreka por eso le insisto considera usted válidas

hasta ahora para conseguir estos objetivos o es necesario dar una vuelta y cambiarlas porque todos queremos que se dedique ese dinero al euskera a su protección

es parte en el patrimonio cultural parte fundamental de nuestro patrimonio cultural pero quizá
a lo que se está dedicando pues no sirva para nada porque los efectos están ahí en la calle muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erkoreka jauna zurea da hitza

y que además de articular el entorno a la idea de que hay que acabar con el autogobierno vasco como empezaron ayer en el senado quieren acabar también con el euskera a través de esa fórmula tan frecuente por otra parte en el discurso del partido popular del

pero estamos absolutamente en contra de que se tome una sola medida para su promoción e intensificación esa es la política tradicional del partido popular siempre fíjese sobre las estadísticas yo no tengo nada que ver con la organización de la diputación foral de álava que lo ha traído usted aquí y eso

consejero pero fíjese con respecto a las estadísticas a las que usted se refería efectivamente

pero no hay una evolución sustancial estamos entre el doce por ciento y el diecisiete por ciento en los últimos cinco años de las consultas que se hacen en euskera usted quiere decirme que

hay que eliminar la presencia de los servicios de atención al público de la persona capacitada para prestar servicios en ambas lenguas por favor este es un aspecto que no tiene que ser objeto de modificación esto está perfectamente diseñado porque no sabemos qué concentración se va a producir

aman el euskera pero no quieren que se use y no quieren tomar medidas de promoción ese es su problema eterno no de ahora secular
de toda la vida ya vemos por dónde va la campaña electoral gracias eskerrik asko erkoreka jauna eta momentu honetan